decir algo para que usted termine por saber y yo también

yo creo que se puede definir todo en una frase queremos que bajen los precios

queremos que bajen los costes de los créditos hipotecarios y para que eso suceda la política debe intervenir puede intervenir puede resolver es más la política hoy

instrumento o herramienta de organización de la sociedad si no más allá de la política

la ciudadanía los afectados en un tono más particular están absolutamente legitimados para pedir ese cambio y para pedírselo a la política cuando en este momento el sistema financiero de este país está siendo soportado por el dinero público

después de un rosario de fracasos en el que ha incurrido por errores abusos y excesos sistema financiero y que con dinero público detrayéndolo de otras posibilidades hoy se está tratando de capitalizar a ese sistema financiero

para plantear que una de las herramientas uno de los instrumentos de las figuras por las cuales qué es el índice de referencia de los prestamos hipotecarios pueda ayudar a este problema a este drama

que está en las economías domésticas que está en la dificultad de muchos ciudadanos y ciudadanas que han tomado créditos para poder tener una vivienda que ni tan siquiera tiene empleo ese drama

que es un problema técnico en que hay que perderse en referencias

en ordenes y en disposiciones no sé cuál es su interpretación su planteamiento su posición en la política no sé cuál es a no ser que

a intentar usted sí mezclarlo todo

en la solución de un problema de un drama humano social

a miles a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas ese es el problema de fondo cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que no tienen economía propia para poder soportar unos créditos que tomaron en su día unas hipotecas que tomaron en su día a unos precios absolutamente especulativos en un momento en el que esas entidades financieras toman dinero con unos precios públicos

de hacer una política una función de carácter social y resolver ese problema este es el problema de fondo señor damborenea

al servicio de la política y la técnica no como hace usted para enmascarar

aquí hay un problema político esta es una cámara política y el problema político es si le damos la espalda a miles de ciudadanos en el país vasco o si estamos con ellos

y que las fechas no son la solución nunca para nada las fechas

que se pueden adelantar y que se pueden atrasar y si este gobierno hubiese tenido la voluntad su gobierno el gobierno del partido popular de haber establecido un índice de los prestamos hipotecarios hace tiempo que lo tenía que haber hecho menor de otro tipo en estos momentos estaríamos

más para tratar de defender una negociación de créditos hipotecarios que pueda permitir un alivio un respiro a muchas economías domésticas a muchas economías familiares este es el problema de fondo y su gobierno mientras tanto juega con el calendario pero no juega con la solución

este es el asunto que estamos tratando hoy aquí y si usted quiere decir algo sobre eso dígalo mire el problema suyo no soy yo el problema suyo no es el partido socialista el problema suyo si tiene conciencia y sensibilidad social es el problema de la ciudadanía un problema común a miles de ciudadanos un problema que afecta a muchas personas y esas personas necesitan una solución un tratamiento una posibilidad de arreglar ese problema y la política puede dar si quiere darlo y la política está en condiciones de exigir al sistema financiero que ayude y que trabajen la línea y en la orientación de la política

financiero de la política si usted quiere mojarse en eso hágalo sino ocupe su tiempo como hace muchas veces enredándose en palabras que no llegan a ningún sitio y dando la espalda al problema de verdad que es el que está en la calle

muchas gracias señora presidenta señor carro qué índice aplicamos

no sabe qué índice hay que aplicar las cajas están locas no saben como funcionar

por favor se suponía que ustedes eran un partido un poco serio se suponía

el tipo de interés que tiene kutxabank

sabe cuantas han hecho las cajas y cuántos los bancos multiplique usted por ocho

y luego hágase la pregunta de por qué los ciudadanos vascos prefieren hacerse las hipotecas en bancos que en cajas

y usted qué quiere encarecer a todo el mundo eso las hipotecas eso es lo que nos ha venido aquí a plantear por si acaso el gobierno de españa no sabe hacer las cosas oiga

saben leer saben leer saben lo que dice la orden saber que dicen que hasta el seis de octubre

a qué lo saben saben leer los dos o no saben

o el problema es que no sabemos leer para venir aquí a decir que es que el gobierno del pp

la ley que dice del partido socialista si ustedes la votaron si son responsables directos de todo

por supuesto víctimas de las políticas del partido socialistas apoyadas todas por el partido nacionalista vasco en la época de zapatero

de esa banca especulativa que robaba a los ciudadanos pero quién gobernaba ustedes qué hicieron nada

no había desahucios no había desahucios

cuando se planteaban estos temas pero qué nos viene

la sensibilidad social no existe no existe no hace falta demostrarla tomando medidas

no se preocupe usted con nuestra sensibilidad social nosotros sí las estamos tomando

usted viene aquí exigiendo que se adelante los plazos previstos en una orden del gobierno del pp porque supongo que le parece buena la orden sino digo yo que usted no nos vendría aquí a instar a que se ejecute antes de lo previsto en la propia orden

pero reconózcale al señor guindos que tiene más sensibilidad social que usted que hace un año que aprobó esa orden

con los plazos que tiene y por favor dejen de engañar y mentir a la gente

usted sabe y el señor carros sabe que cuando estén los nuevos tipos de referencia la gente va a seguir pagando los mismos intereses que tiene pactado con su banco o su caja como tiene usted hoy gente que paga el mibor según el mibor que era lo que tenía pactado

hace muchos años deje usted de mentir porque ya no es desconocimiento lo suyo

es que baje los tipos de interés de los bancos y de las cajas

hace eso porque no hemos conocido ninguna ley suya

a fijar los tipos de interés de los bancos ni de las cajas ni siquiera lo han planteado por qué no lo plantean en el congreso de los diputados a ver

y dígale que es un ladrón y que baje los tipos de las hipotecas

con los tipos de las hipotecas de kutxabank si lo tiene muy fácil mayoría absoluta en el consejo

a hacer el discurso del paripé a quedar bien y luego a robar allí como está diciendo usted que están haciendo sí

sea coherente quiere bajar los tipos de kutxabank usted lo puede hacer eskerrik asko

entiendo que tiene usted un marrón hoy muy grande pero no por mucho que grite por mucho que diga que he robado porque ya revisará yo no he dicho jamás eso pero hay una realidad

guindos hizo esa ley vamos a ver

rajoy tomó posesión el veinte de diciembre de dos mil once esta ley se pública en el boletín oficial del estado el veintinueve de octubre

la hicieron los miembros del partido socialista obrero español no guindos ni tan maravilloso ya sé que tiene un marrón hoy muy grande

desde el veintinueve de abril del dos mil trece hay unos índices

y se utilizan ahora otros índices pues que ya están más acordes a nivel europeo

los bancos van a seguir cobrando los índices que tengan puestos en sus cláusulas

este régimen transitorio que no ha hecho porque no quiere enfrentarse a ese marrón

es suficiente y dé solución a esos índices a los que no tienen un índice alternativo

y aquellos que ya tenemos índice alternativo cuándo lo aplicamos como no ha habido periodo transitorio y en esa disposición ya pone

y no pueden ya utilizar esos créditos los vigentes

no tenemos ningún problema en hablar de kutxabank en que aparezca por cualquier sitio

de entidades que han combinado su actividad financiera con una profunda vocación social y si el gobierno no responde no se preocupe que estoy seguro que kutxabank seguirá haciendo un esfuerzo como ha seguido haciendo el esfuerzo

yo creo que eso eso está ahí pero lo que tampoco vamos a pretender es que

pues ha tenido que enfrentarse al famoso informe stress test

es que estén todos en el mismo barco es decir que todas las entidades bancarias se les aplique los mismos criterios utilicemos la misma regla de medir para todos no tenemos ningún problema en hablar de kutxabank cuantas veces ustedes quieran y de las cajas vascas no hay ningún problema

es simplemente que apliquen la ley algo que no han hecho ya sé que hoy tenían y le perdono todos los gritos lo que me ha llamado da igual

porque vamos haber necesitado ya desde abril de dos mil trece un año han tenido año y medio desde que rajoy tomó posesión

por eso les hemos dicho oiga usted aquí tiene el euribor más uno porque en año y medio es que han sido incapaces de encontrar nada pues sin más eskerrik asko

muchas gracias presidenta lehendakari señoras y señores parlamentarias buenos días

cumplimiento de las iniciativas parlamentarias quizá pueda ser considerada una asignatura pendiente de las relaciones parlamento gobierno desde luego aquí

en muchos otros parlamentos ya se consideró en el proyecto de reforma del reglamento del parlamento vasco de mil novecientos noventa y ocho que las decisiones parlamentarias del tipo moción fueran informadas ante comisión relación a su cumplimiento por parte del gobierno aquella reforma no prosperó pero creo que ahora estamos haciendo una labor

desde luego la ley es la máxima expresión del acto parlamentario pero la aprobación de las proposiciones no de ley que son el instrumento parlamentario por excelencia

y resoluciones fruto de debates monográficos en pleno y comisión suponen un conjunto de decisiones y mandatos parlamentarios de diversa índole y dirigidos a diferentes autoridades públicas fundamentalmente el gobierno vasco que han de ser

esencial para dar relevancia para dar transparencia a esta declaración

este parlamento tiene otorgada la máxima representación del conjunto de los vascos

además de la legislativa esta parte fundamental de trabajo parlamentario es una garantía básica del funcionamiento del estado de derecho basado en la separación de poderes

y sus decisiones adquieren la relevancia fundamental la expresión máxima de exigencia y la constatación del esfuerzo por el acuerdo y la negociación

de que las decisiones que surgen de los debates de proposiciones no de ley de mociones o de debates monográficos o de comunicaciones del gobierno en sesiones de pleno o comisión con la aprobación de las correspondientes propuestas de resolución se quedan en un puro debate y en la publicación en el boletín oficial exigimos un seguimiento continuado de todas esas decisiones parlamentarias nos lo exigimos primero a nosotros mismos y hacemos efectivo ese control parlamentario pero se lo exigimos también al principal destinatario

al gobierno que presente un informe sobre el grado de cumplimiento dos veces al año al principio de los periodos de sesiones y que explique en la cámara cómo forman parte de una actuación normal que hace tiempo

en el propio reglamento parlamentario y en la propia legislación

a la cámara forman parte de esa necesidad de esa actuación normal ordinaria que desde luego tiene que estar ahí no ha sido así y por ello es bueno que podamos acordar un planteamiento de estas características entre todos hacerlo ahora a partir de esta iniciativa que

y las cantidades suelen ser un buen ejemplo gráfico para ver el grado de necesidad de hacer un control de la actividad

además de lo que se aprobará en este pleno último del actual período de sesiones se ha aprobado y los números están ahí

proposiciones no de ley veintiséis mociones consecuencia de interpelación y ciento cuarenta y dos resoluciones en tres debates monográficos

casi trescientos para ser concretos doscientos noventa y nueve mandatos o declaraciones parlamentarias que tienen al gobierno vasco como principal destinatario de instancias de propuestas de mandatos o de encargos y eso

informado y debe de ser clarificado se establecen en estas iniciativas plazos que cumplir informes que realizar propuestas que elaborar por el gobierno o actuaciones que desarrollar y el gobierno debe de analizar

que cumpla además esta fórmula de dar cuenta del grado de cumplimiento de las proposiciones de las mociones de las resoluciones

oportunidades oportunidades de explicación de explicar muchas veces las dificultades

esas dificultades la necesidad de más tiempo que pueda requerir alguna de las actuaciones

quizá también el poner de manifiesto los errores o las incorrecciones que muchas veces tienen algunas de las disposiciones de los mandatos de las declaraciones de la cámara muchas veces también hablar de la falta de recursos en relación con algunos encargos propuestas por qué no

o muchas veces también y lo hemos visto el cambio de circunstancias de condiciones objetivas en relación con el cumplimiento de muchas cuestiones en tiempo

que el mandato parlamentario siga vigente pero haya que dar alguna explicación haya que aportar algún criterio nuevo

la redacción de un informe como la comparecencia ante la cámara será un buen momento para despejar todas esas dificultades

de la misma manera que también para reconocer incumplimientos en el caso de que existan también esos

de las resoluciones son fruto de las reivindicaciones son fruto de las propuestas de las sugerencias que recogemos los grupos parlamentarios de los ciudadanos de este país no de lo que se nos ha podido ocurrir a los grupos parlamentarios de lo que inventemos en los despachos de los grupos parlamentarios no lo que forma parte de las partes dispositivas que se aprueban

de lo que los grupos sociales nos vienen a decir a reclamar al parlamento o de las necesidades que detectamos a través de lo que esos grupos de los que esos ciudadanos y ciudadanas nos dicen es decir

las propuestas no legislativas son una de las mejores expresiones de la participación ciudadana en la toma de decisiones en los parlamentos y desde luego ello hay que reconocerlo hay que respetarlo y hay que cumplirlo es decir todas estas y la gran mayoría de las proposiciones de no ley de las mociones y de las resoluciones que forman parte

forman parte también de esa participación ciudadana que nosotros

muchas veces como mandatos como encargos al gobierno bien yo finalizo yo creo que la cuestión está clara yo agradezco a los grupos enmendantes al partido nacionalista vasco a upyd sus aportaciones que han fijado que han enriquecido lo establecido en la proposición inicial la proposición inicial era marcar un terreno de juego pues ahí tenemos que jugar se ha establecido un plazo

este encargo parlamentario y que ese sea enero de dos mil catorce y a partir de ahí a partir de enero de dos mil catorce desde luego enero incluido pues cumpliendo los informes haciendo bien los informes las dos veces al año

entiendo que el gobierno que tiene que trabajar en serio este tema o sea que eso está claro tiene que preparar también para preparar en serio

esa información sobre las trescientos o más de trescientos quizá en el próximo periodo de sesiones propuestas proposiciones resoluciones mociones

para ese mejor cumplimiento lo necesario todo lo necesario para el trabajo informático administrativo en red y en ese sentido para la elaboración de los informes y veo también

y desde luego nos esperábamos que eso surgiese en el debate parlamentario a la hora de presentar la iniciativa veo lógico y pertinente que el gobierno una vez presentado ese informe de situación dé cuenta de él ante la comisión de instituciones responda a los grupos del cumplimiento

en definitiva una enmienda de transacción que desde luego yo creo que puede ser aprobada por todos los grupos parlamentarios así lo espero creo que es una cuestión de avance

en primer lugar que tiene tres puntos el primero instando al gobierno que a partir del dos mil catorce como ya he explicado realice ese informe sobre el grado de cumplimiento de las iniciativas a las que me he referido antes un segundo punto que inste al gobierno a que actualice a que

para hacer ese seguimiento y ese control esa coordinación de los departamentos del gobierno en relación con esa aprobación de las proposiciones no de ley ya les digo he hablado de

cinco meses que llevamos trabajando es decir hay que hacer un control serio riguroso exhaustivo efectivamente eso requiere medios y requiere una capacitación que

diciembre de dos mil trece para que se realice y ya se instale de una manera definitiva en la acción del gobierno y así mismo efectivamente en relación con las enmiendas también decía instamos

en la quincena posterior a la entrada en el registro de la cámara del informe referido comparezca ante la comisión de instituciones seguridad y justicia un representante del ejecutivo para explicar el citado informe y para responder

responsable bien puede ser el portavoz del gobierno como indicaba el señor maneiro también puede ser el representante y el responsable de las relaciones con el parlamento vasco o desde luego

la interlocución entre el gobierno y el parlamento en relación con dar cuenta de esta cuestión nada más muchas gracias señora

en nuestra opinión en fin no debería ser necesario aprobar una proposición no de ley para instar al gobierno a que cumpla las proposiciones no de ley

no hace falta decirlo el gobierno está obligado a cumplir todas aquellas proposiciones no de ley o mociones que se aprueben en este

es cierto y está comprobado que en numerosas ocasiones estas proposiciones no de ley estas mociones estas resoluciones efectivamente y finalmente no se cumplen pues

mal todo lo contrario nos parece bien que le recordemos al gobierno que debe cumplirlas por cierto incluida esta también también esta proposición no de ley tiene que ser

en todo caso es cierto también que la proposición no de ley planteada por el señor barrio no proponía únicamente instar al gobierno

que tome en consideración y cumpla las proposiciones no de ley sino que iba más allá

pedía la elaboración y la presentación de un informe en la cámara que explicara el grado de cumplimiento de las proposiciones no de ley mociones y resoluciones aprobadas para que a través de ese informe explicara los pasos que se han dado lo que no se ha cumplido o lo que no puede cumplirse por lo tanto esta proposición no de ley planteada por el señor barrio digamos que iba un poco más allá de lo mínimo que nosotros compartimos y ya puestos y una vez leída la proposición no de ley lo que nosotros hicimos fue presentar una enmienda de totalidad

proposición no de ley del grupo popular es decir hicimos nuestra aportación para mejorar esa iniciativa original a través de esta enmienda de totalidad y nosotros lo que planteábamos es que

siguiente a la recepción de ese informe elaborado por parte del gobierno vasco pues el portavoz del gobierno vasco nosotros proponíamos el portavoz del gobierno vasco pueda comparecer ante la comisión de instituciones seguridad y justicia para explicar el citado informe y los grupos tuviéramos también

de realizar las preguntas o los requerimientos que considerásemos necesarios finalmente no se ha incluido que sea el portavoz del gobierno vasco creo que tiene una importancia relativa pero en todo caso

se ha incluido en esa enmienda transaccional que finalmente hemos firmado sí que es cierto que suena extraño el punto número dos de la enmienda de transacción que

esto de que pidamos al gobierno vasco a que para diciembre de dos mil trece

y coordinación con los distintos departamentos del gobierno de las proposiciones no de ley mociones y resoluciones aprobadas en el parlamento parece ser que esto no existe y que

no hemos tenido obviamente ningún problema en incluirlo pero sí que suena extraño que a día de hoy todavía haya que llevar a cabo

un deber más que le ponemos al gobierno en fin ya digo ahí está también recogida nuestra aportación creo que va a ser una enmienda de

y obviamente ahora solo queda esperar que el gobierno vasco cumpla también esta proposición no de ley creo que es un buen paso para poder controlar más y mejor a este gobierno en fin a este gobierno y a los que vengan en el futuro nada más más que agradecer

berresten dugu con la aprobación de esta de ley con la aprobación de la enmienda a la que hemos llegado el grupo proponente y los dos grupos enmendantes esta cámara hoy ratifica el compromiso ya adquirido por el gobierno urkullu el portavoz del

hizo público el compromiso en esta cámara en febrero en la presentación de las líneas estratégicas de su departamento en concreto

uno de los capítulos de la ley de administración pública vasca que el gobierno se ha comprometido

abordará la transparencia el derecho de acceso a la información y participación aspectos básicos de las vertientes de lo que se ha venido en llamar buen gobierno resumiendo cinco de los aspectos básicos que abordará ese capítulo la regulación del principio de publicidad activa establecer el marco de derecho de acceso a la información pública la transparencia en la acción

el contenido básico de ese capítulo de transparencia como decía gure taldearen ustez eusko abertzaleak taldearen ustez

señor barrio la iniciativa que ha presentado es una iniciativa razonable

y la izquierda tiene tan pocas ocasiones de poder acompañarles que en esta ocasión lo vamos a hacer además

porque todo esto estaba establecido confiemos en que la informática

que suele ser ya sabe problema por el cual casi nunca se llega en el momento adecuado pero en fin está usted lleno de buenos

objetivos y propósitos y nosotros lo vamos a apoyar

eskerrik asko presidente andrea visto la bondad del señor txarli prieto con respecto

quiero ahondar en algunas cuestiones que me parecen importantes y que

respetar y asumir la voluntad popular transparencia estrechar la relación entre las juntas generales y la sociedad vizcaína y evitar

gaur bai esan duzula zure interbentzioan hablar de la participación ciudadana

ekimena planteatu duena izan da sí que me gustaría formularle una pregunta y

de españa porque usted ha hablado aquí de doscientos noventa y nueve mandatos efectivamente la mayoría creo que entre el noventa y cuatro o noventa y cinco por ciento son mandatos que se dirigen al gobierno vasco pero qué pasa con las que se le solicitan al gobierno español y le voy a nombrar unas cuantas

esta cámara dijo no a la lomce reforma laboral esta cámara a la reforma laboral recortes esta cámara dijo no a los recortes laborales y sociales copago

esta cámara dijo no al copago esta cámara pidió también que las fuerzas de seguridad salieran de euskal herria

lo solicitarán al gobierno de españa porque si es que estamos pidiendo si estamos pidiendo al gobierno vasco

que diga qué es lo que ha hecho de lo que esta cámara le ha planteado

tendrán que pedir al gobierno de españa que respete las decisiones de este parlamento besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna erantzunen txandan sartuz

brevísimamente desde el escaño con su permiso en primer lugar

a todos los grupos enmendantes o no el apoyo a la iniciativa desde luego con los enmendantes

el apoyo a la iniciativa mire señor agirrezabala usted se empeña en sacar de contexto el debate

como usted bien sabe yo controlo o impulso en este caso la labor de este gobierno y las decisiones y defiendo las decisiones que se toman en este parlamento con mi iniciativa incluso las que yo no voto las que yo estoy en contra pero creo que se hable sobre ellas y el gobierno informe y el control que usted exige

rekondo ese es el control que ustedes

en el congreso de los diputados deberá realizar desde luego yo desde aquí no puedo impulsar no puedo controlar la labor del gobierno de españa yo tengo que impulsar o controlar la labor del gobierno vasco y esa es mi obligación desde luego en ese sentido yo le invito a usted a que eso

a su grupo parlamentario que se conoce no lo hace yo quiero simplemente resaltar el avance

se van consiguiendo cotas poco a poco los plenos de control por ejemplo

andadura este parlamento la anterior legislatura fue la noveno pues durante ocho legislaturas no ha habido por decirlo así plenos de control con la agilidad y con

también las comisiones de investigación parlamentaria se han abierto es decir yo creo

que son avances y esto es un avance yo creo que es lo que hay que tener en cuenta en relación con la cuestión de que

de control de impulso eso está bien nos alegremos además y compartimos que sea una cuestión asumida y exigida por el gobierno nosotros le hemos puesto deberes primero dos informes al año y

en relación con esos informes eso va un poco más del compromiso del gobierno desde luego lo reafirma lo afianza pero lo amplía en relación con dos y dos

también es un avance que hay que tener en cuenta y que desde luego lo que estamos satisfechos

alde batetik barrio jaunari señor barrio usted decía en su primer turno que las iniciativas

y que son las mejores expresiones de la participación ciudadana la verdad es que es curioso

que pertenece al partido que está gobernando en base a la aprobación de decretos ley treinta y seis decretos ley aprobados en año y medio señor maneiro usted decía que es curioso que no debería ser necesario instar al gobierno a que se cumpla lo que aquí se aprueba no se está instando porque el gobierno ya cumple y le he leído el compromiso del gobierno vasco

a dar cuenta de lo que hace y precisamente es eso lo que pedimos que sistemáticamente se haga eso agirrezabala jauna zuri bi apunte egingo

eskerrik asko sí señora presidenta solo para
que conste una aclaración al señor agirrezabala y es que en

iniciativa popular hubo una primera posición en la mesa del parlamento no se tramitó hubo una reconsideración

el grupo socialista votó a favor de que se tramitara esa iniciativa

estar en esa junta de portavoces por lo tanto como esta es una cosa que se ha repetido en muchas ocasiones por usted y por otros no sé con qué interés pues que quede claro cuál fue nuestra posición muchas gracias

mahaiburu andrea eta eserlekutik zure baimenarekin al señor barrio mire usted me dice que las últimas cuestiones que le formulo es decir aquellas que van dirigidas al gobierno de españa me dice que las saco de contexto es decir

la misma legitimidad tienen aquellas que se les piden al gobierno vasco como se les piden al gobierno español por lo tanto esperaba de usted una respuesta no la que me ha dicho dígale a usted a rafa larreina o dígale si no que esperaba que ustedes también serían coherentes con lo que hoy han traído aquí que es

grado de cumplimiento de aquello que ha aprobado este parlamento por lo tanto

a su gobierno que todos los casos que le he dicho anteriormente

sí gracias presidenta la corrupción política es vomitiva
como es vomitiva los representantes políticos además de decir que es vomitiva lo que debemos hacer es impulsar reformas legales para luchar más y mejor contra ella de manera más contundente para evitar dejar resquicios

y a los que solo se quejan pero no actúan protegiendo con esa inacción a los corruptos los casos de corrupción están generando una profunda desafección desconfianza en la ciudadanía hacia el propio sistema democrático y hacia los propios partidos políticos indispensables en una democracia a los que se acusa de permisividad

según el barómetro global de corrupción de transparencia internacional españa ocupa el puesto treinta y uno de una lista de ciento ochenta y tres países y recalca

la necesidad de despolitizar las distintas instituciones financieras judiciales y supervisoras y la necesidad también de reformar la ley electoral ese informe critica además

electorales y de todos los órganos representativos ese informe califica el sistema español como de bipartidismo imperfecto

tienen interés en mejorar profundamente el estado de cosas no podemos mantenernos de brazos cruzados ante el avance de la corrupción política y el desprestigio creciente de la práctica totalidad de las instituciones democráticas

algunas medidas se han tomado a pesar de que algunas reformas legales se han adoptado algunas de ellas gracias al impulso de upyd en el congreso de los diputados

porque hay margen y algunas de ellas las planteamos en esta iniciativa que registramos en su momento y defendemos ahora gracias a una interpelación de upyd

es posible imputar penalmente a un partido político gracias a la ley orgánica siete barra dos mil doce de veintisiete de diciembre

que los partidos políticos y los sindicatos estén sujetos directamente a responsabilidad penal fue sin duda un paso importante pero no suficiente el pasado día ocho de marzo se aprobó una moción

en el plazo de tres meses impulsar las reformas legales que sean necesarias en relación con la persecución y la prevención de la corrupción política a fin de por un lado sancionar penalmente mediante un tipo delictivo autónomo la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social

actualizado dos establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos aplicable tanto a la financiación ordinaria como

en el caso de que se descubrieran bienes fondos o patrimonio oculto cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada en virtud del régimen legal de financiación actualmente vigente y en coherencia con la contabilidad formulada y presentada a fiscalización el tribunal de cuentas tres incorporar a nuestra legislación penal el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado o injustificado de un político en relación con los ingresos que por obligación legal

todo esto es lo que se ha incluido en la transaccional que nosotros hemos firmado porque fue esto en concreto estos tres puntos lo que se aprobó en esa moción del pasado mes de marzo y esta es la moción que traemos a votación y debate

por las razones que ya digo porque este último punto no se aprobó en aquella moción de marzo del año presente en todo caso nosotros insistiremos en defenderlo cuando toque proponíamos el reforzamiento de la responsabilidad de los políticos en el desempeño de sus cargos

sancionando a los gestores públicos que bien de forma dolosa

hayan causado por actos u omisiones contrarios a la ley daños patrimoniales a los bienes

incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo contemplando la posibilidad de un tipo específico de acción popular que permita iniciar los correspondientes procedimientos judiciales como digo es una moción que ya se aprobó el día ocho de marzo pero que por cierto el gobierno de españa no ha cumplido esta es una de esas mociones que el gobierno de españa tiene pendiente cumplir porque en aquella moción del pasado marzo del año dos mil trece se le dio un plazo de tres meses que ya han vencido la traemos a este parlamento porque también desde aquí debemos posicionarnos claramente contra la corrupción política y contra la impunidad vomitiva y porque efectivamente ya han pasado los tres meses desde que esa moción se aprobó sin que el gobierno de españa haya tomado ninguna iniciativa

conviene indicar que no existe en nuestro ordenamiento un delito que castigue la financiación ilegal por parte de los partidos políticos en los casos de la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento injustificado de políticos existe una dificultad en la actualidad insalvable en muchas ocasiones para acreditar

el origen ilícito de fondos proponemos por lo tanto la tipificación de un delito específico de financiación irregular aplicable tanto a la ordinaria a la electoral en el que incurrirían los propios partidos políticos a título de autor directo en el caso de que se descubran bienes fondos o cualquier patrimonio cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada no se trata de que se pueda terminar condenando a un partido político por delitos que demuestren que se ha financiado ilegalmente si no que la financiación ilegal sea considerada como un delito respecto a los cargos públicos selectivos se propone la necesidad de incorporar a nuestra legislación penal el conocido delito de enriquecimiento ilícito

cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado de un político en relación con los ingresos que por obligación legal debe declarar públicamente deberá entenderse que se produce ese enriquecimiento injustificado tanto por bienes o derechos como por condonación o cancelación injustificada de obligaciones a nadie habría de extrañar que tuvieran que estar obligados a dar cuenta de sus bienes al terminar su función y que de la eventual falta de justificación o incoherencia

incluso de tipo penal finalmente como decía proponemos reforzar el régimen de responsabilidad de aquellos gestores públicos que hayan causado daños

en la enmienda de transacción porque fue una de las medidas que en el congreso de los diputados aunque nosotros lo defendimos y la presentamos

por el resto de partidos políticos en definitiva estas son las nuevas medidas que nosotros proponemos ahí está la enmienda transaccional

firmar con el resto de partidos políticos que han presentado enmienda esta iniciativa supone un avance mayor del que ustedes imaginan porque esta iniciativa y en concreto la moción de tres puntos no fue apoyada en absoluto por todos los grupos del congreso de los diputados

esta moción y gracias a ello salieron aprobados estos tres puntos pero

a favor en aquel debate del pasado marzo del año dos mil trece con lo cual nos parece ciertamente un paso interesante que una transaccional con este contenido pueda ser aprobado en este parlamento vasco y sirva también para instar al gobierno central a que haga

para acabar con la vomitiva corrupción política debo decir en todo caso que esta enmienda de transacción que nosotros hemos firmado

esas medidas que están ahí planteadas no son suficientes y se pueden hacer

se pueden hacer más cosas pero en todo caso estamos satisfechos porque

enmienda de transacción con el resto de grupos a los que nuevamente agradezco nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta egun on buenos días a todos otra vez

vivimos tiempos complicados en los que desayunamos todos los días leyendo periódicos o comemos y cenamos viendo en los telediarios lo que es una secuencia

de corrupción política la corrupción cualquier corrupción es inadmisible resulta insoportable por pequeña que sea

y a nosotros a todos nosotros empleados de los ciudadanos políticos

y claro que este panorama produce verdadero asco

no nos engañemos la corrupción está ahí existe y lamentablemente existirá en todos los órdenes de la vida en la política

y dinero allí donde la ética el rigor la independencia la responsabilidad la nobleza y la dignidad se aparcan y se dejan arrastras vislumbradas por la codicia el dinero en definitiva por la ausencia de escrúpulos

es aquel que reparte botines donaciones o regalos quiero también decir por sacarle alguna lectura positiva a estas

y día también que podemos sacar como lectura positiva el hecho de que

estamos conociendo quién cómo y por qué determinados personajes funestos se acercan y se aprovechan del poder y sucumbieron a la tentación de enriquecerse porque hoy afortunadamente nada escapa a la verdad tarde o temprano

al menos están quedando como lo que son auténticos piratas de la política

en forma primero de reprobación social indignidad después

ingreso en prisión hay que combatir y erradicar la corrupción con toda la ley con todas las herramientas con que pueda dotarse el estado

siempre que se ha conocido un caso de corrupción en españa ha habido una respuesta judicial el reproche moral la arcada ética de nuestra sociedad

el poder judicial la fiscalía actúan pero deben de actuar con todo rigor cada vez con más rigor ante estas conductas y también por eso el estado de derecho en su conjunto debe de dar una respuesta rápida y contundente ante la corrupción

también tiene que evitar una condena pública sin sentencia para el que no es corrupto ni lo ha sido nunca la pregunta que cabría hacerse es

al poder de los que nos habíamos dotado hayan fallado durante tanto tiempo y toda esta gentuza haya podido robar el dinero de todos los ciudadanos qué es lo que ha pasado

y puesto que muchas cosas han fallado la gran tarea el gran reto al que nos enfrentamos es cómo ponemos los medios no vuelva a ocurrir y no me refiero a que no vuelvan a aparecer casos de corrupción que como he dicho antes los ha habido los hay y los habrá el caso es por un lado

y por otro cómo reaccionamos hasta qué punto adoptamos todas las medidas contundentes de reacción a nuestro juicio a mí juicio esa es la cuestión

con estrechez de miras evidentes no saben darse cuenta no quieren o no pueden de que la corrupción no es patrimonio de unas siglas políticas determinadas la política en este caso como en todo

la corrupción no es patrimonio ni del partido popular ni del partido socialista ni del partido nacionalista vasco ni de upyd ni tan siquiera de bildu la corrupción es un problema común

a todos que aquellos que tienen una responsabilidad de poder porque entorno al poder entorno a las decisiones políticas sea cuales fueren

las de las diputaciones ayuntamientos consorcios de aguas y lo que ustedes quieran confluyen intereses económicos y entorno a esa capacidad confluyen intereses presiones adjudicaciones ese es el caldo de cultivo de la corrupción una corrupción que navega bien

que se siente cómoda en la opacidad en el barro que impide ver los tramites las adjudicaciones las gestiones los intereses una corrupción que también navega mal en la transparencia está incomoda en la claridad en la sinceridad de con quien me reúno qué intereses tiene qué adjudicaciones otorgan

y el control la colaboración el pacto también en esta materia es lo que nos demanda la sociedad una sociedad cansada y harta y queremos que ese es el mejor antídoto frente a los corruptos esa es la principal tarea que tenemos todos los aquí presentes para impedir que esta lacra se extienda entre nosotros como una tinta de calamar que nos mancha nos borra a la inmensa mayoría de quienes nos dedicamos a la política con honestidad y compasión

hace ya dos siglos defendía como inherente a la democracia la necesidad de que las finanzas de la unión

y con la sencillez con que llevaría un comerciante los libros es decir aplicado a nuestros tiempos que cualquier ciudadano conozca y consulte

cualquier cosa relacionada con la cosa pública no hay mejor remedio contra la corrupción que anticiparse a ella que estar prevenidos y poner los mecanismos a nuestro alcance para impedirla pero sin olvidar

para que el que no tiene escrúpulos pueda también navegar

además de los medios de prevención la reacción tendrá que ser contundente y creo sinceramente que tenemos todos la obligación de remar en la misma dirección la de potenciar el control de nuestra actividad y la transparencia total de nuestras acciones públicas todos tenemos la obligación de recuperar para la política el significado que tiene la nobleza del servicio público

se ha impuesto la idea de que el sistema no funciona y de que todo es corrupción

que trabajan para el bien común podremos recuperar también

tenemos todos la obligación de recuperar la confianza de la ciudadanía en la política porque sin esa confianza la democracia se resiente

y por eso me revienta me revientan determinados debates del y tú más hacer bandera partidista de la lucha contra la corrupción

tiene un recorrido muy corto titulares informativos nada más

sin excepción y tengo que confesarles que la corrupción me duele la que afecta a mi partido aun más porque es el mío

para defender al ciudadano como entiendo que a ustedes les afecta y les importa más la corrupción cuando les afecta a sus propios partidos

y denunciar a quien mete la mano en la caja aún estamos también por ver si hacemos una autocrítica aún estamos también por ver que un partido político sea el que denuncie

suyo por corrupción pero todo eso también se andará es el momento de aplicar medidas útiles algunas de las contempladas ya en la proposición no de ley de origen y que han tenido reflejo el acuerdo de transacción y hay que recordar conviene hacerlo que hay cosas que se están haciendo que la crítica podrá ser por la tardanza pero que hay cosas que están haciendo en el debate de investidura del veinte de febrero del dos mil trece

rajoy anunció una ley de transparencia una ley orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos políticos una ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas unas reformas de las normas que regulan el funcionamiento de ambas cámaras también

a estos casos de corrupción iniciativas que como mejor argumento a la lucha del gobierno contra la corrupción

hoy ya está en tramitación un proyecto de ley de transparencia con un amplio consenso en el congreso de los diputados una reforma de la ley orgánica de control de la actividad económica o financiera de los partidos políticos

y deudas a los partidos políticos que no puede donar a los partidos políticos en virtud de esta ley ninguna empresa que contrate con ellos o forme parte de su grupo empresarial una reforma de la ley orgánica del tribunal de cuentas una reforma de la ley de contratos del sector público un proyecto de ley regulador

y sí una reforma del código penal donde los partidos se someten a una responsabilidad penal suprimida en el año dos mil doce aumentando las penas por ocultación

que crea un tipo agravado de delito fiscal y contra la seguridad social que eleva a penas ampliando con ello el plazo también para la prescripción

omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos de sus cuentas y patrimonio social financiación ilegal y enriquecimiento injustificado

y electivos amén de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar el tiempo de respuesta ante la actuación delictiva termino ya señora presidenta compartiendo con ustedes una satisfacción

de acordar una proposición no de ley en los términos acordados pero una satisfacción que será completa cuando todos seamos capaces con nuestros hechos y con nuestras acciones de empezar a recuperar la confianza de los ciudadanos hoy mermada

eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on guztioi este es un debate que desde el grupo socialista queremos abordar alejados de la lucha partidaria porque estamos convencido de que si realmente queremos avanzar deberemos hacerlo todos juntos de manera objetiva decidida y continuada como se suele decir sin cuartel y además por eso precisamente es bueno

entre todos los grupos enmendantes y el proponente porque creo que debemos de compartir por lo menos algunos puntos de vista comunes

haciendo varias consideraciones previas que yo creo que son obligadas primero decir que el abuso de poder de cualquier tipo para su propio beneficio o para un tercero la utilización de su condición de cargo público para su propio beneficio y cualquier conducta que no tenga como objeto el servicio público en su sentido más amplio es condenable

y quiero también aprovechar hoy para reconocer aquí la labor de miles de concejales de diputados de senadores de parlamentarios autonómicos de consejeros de ministros

de presidentes autonómicos y de presidentes del gobierno de españa que han desempeñado y desempeñan sus cargos

lógicamente no hay que olvidar que errar es humano sirven a la sociedad y en euskadi especialmente el oficio de la política para muchos ha tenido hasta hace bien poco

primero por defender los intereses de los ciudadanos pero también por mantener la pluralidad política en este país y el señor maneiro hoy nos ha traído con su proposición no de ley un debate

porque todos los grupos de este parlamento tenemos representación en aquella cámara y hasta donde yo sé todos han presentado enmiendas han colaborado han votado han mantenido sus posiciones y se están dando pasos en el camino correcto

y aquí en la pasada legislatura se empezaron a poner bases de transparencia de control de la acción del gobierno por parte de los ciudadanos de participación pública y que en esta legislatura tenemos ya otras iniciativas en marcha en ese mismo sentido en este parlamento

transaccionada centramos ese tema que estaba exclusivamente circunscrito al ámbito del congreso de los diputados y del gobierno de españa y acercamos el tema a euskadi

esta enmienda tiene también aspectos positivos especialmente el tercer párrafo donde compromete al gobierno vasco en el camino hacía la transparencia y la garantía del acceso de los ciudadanos a la información

no hay que olvidar que sorprendentemente a pesar de diversos declaraciones de diversos miembros del ejecutivo

legislativo que se aprobó el pasado martes en el consejo de gobierno no se incluye ninguna mención a la ley de transparencia

y en el programa con el que solicitó la confianza de la cámara hace seis meses

por eso es por lo que creemos que esta enmienda transaccional también tiene ese aspecto positivo porque goza además del apoyo del grupo de nacionalistas vascos y por lo tanto compromete al gobierno

nosotros una vez culminemos la tramitación en esta cámara de la ley de incompatibilidades si vemos que no hay cambio de posición por parte del ejecutivo vasco traeremos

que la democracia representativa canalizada a través de los partidos políticos es el menos malo de los sistemas políticos ensayados hasta ahora tal y como decía

y esto valía en el siglo veinte y nos sigue valiendo en el siglo veintiuno lo que ha variado de entonces hasta ahora es que tenemos

que permiten perfeccionar la democracia pero quedémonos con una reflexión este sistema la democracia representativa fue precisamente el dique de contención contra los sistemas totalitarios que llegaron al poder aupados por movimientos populista que utilizaron la crisis económica para cargar contra esa democracia

es reforzar el sistema mediante instrumentos de control ciudadano por eso no nos sirven las propuestas de quienes con el lema de reducir la administración además de laminar la educación y la sanidad pretende eliminar los instrumentos eficaces para el control del poder

cuando obtuvo el respaldo de esta cámara para defender la figura del ararteko precisamente como institución que vigile y nos ayude a corregir las actuaciones o inacciones de la administración que lesionan derechos ciudadanos una institución que desde el gobierno central sugieren que se debe eliminar para ahorrar costes nosotros creemos que no se ahorra en costes solo se lamina la protección del ciudadano

a la necesidad de transparencia la eliminación de los tribunal de cuentas autonómicos al contrario creemos desde mi grupo que hay que reforzarlos

e ineficaces lo que nosotros queremos es que cuenten con los recursos para fiscalizar con mayor rapidez

lo que queremos es que amplíen competencias para que tengan también capacidad para controlar la evolución de los bienes de los cargos públicos y en su caso puedan plantear incluso sanciones quienes estamos en la política con vocación de servicio quienes creemos en la democracia

todo ese supuesto ahorro puede suponer un coste mayor para los ciudadanos y no hay más que ver cómo la ausencia de controles eficaces ha provocado conductas absolutamente reprochables que nos indignan a todos sin excepción algunas claramente delictivas

deben ser objeto de sanción como una mala atención a las personas por lo tanto no queremos ni salvadores ni falta de control queremos mejorar la democracia y queremos hacerlo conscientes de la desafección y desconfianza que hay entre la ciudadanía queremos recuperar la credibilidad y la participación de los ciudadanos

y en la tolerancia cero con la corrupción al tiempo que creemos en la necesidad de adoptar medidas contundentes que puedan contribuir a cortar de raíz el problema por ello desde el partido socialista se han propuesto y defendido algunas con poco éxito pero eso no quiere decir que no sigamos proponiéndolas algunas medidas

como es el que las empresas que aparezcan implicadas en un supuesto de corrupción política no puedan contratar con ningún organismo ni empresa pública mientras dure la condena de sus responsables como la de que todos los delitos relacionados con la corrupción política sean juzgados en la audiencia nacional o también como la de prohibir que las empresas puedan hacer donaciones a partidos políticos aquí en euskadi tenemos también una tarea importante por delante

también porque se abrió el camino con el primer código ético para altos cargos una experiencia inédita puesta en práctica desde el convencimiento profundo del gobierno socialista

ha realizado y consolidado con un nuevo código ético porque así se entra en la vía de la conducta del control de las conductas públicas y hemos traído a esta cámara iniciativas para seguir avanzando en esa vía como es la ley de incompatibilidades que discutiremos con todas sus enmiendas a partir de octubre

donde tenemos que mejorar también las reglas internas las nuestras las que no tenemos que esperar a nadie más

que mejoren la transparencia el control y el acceso de los ciudadanos a las tareas que desarrollan los parlamentarios y parlamentarias en esta cámara y como también he señalado nos falta una ley de transparencia que el gobierno se comprometió a traer aunque ahora parece haber renunciado

la ley de incompatibilidades si no cambia el criterio como he dicho antes que yo espero sinceramente que reconsidere la posición la corrupción ha provocado un daño inmenso no a los partidos en sí solo sino a la propia

aprendamos de las lecciones del pasado aprovechemos los instrumentos que nos ofrece el presente para mejorar la calidad democrática y pensemos en un futuro próximo donde los ciudadanos

que mejorar la calidad de vida de todos en ese sentido por lo tanto

de participación ciudadana que faciliten la pluralidad en las instituciones

en las que se hace necesario hacer un parlamento que dependa menos del ejecutivo más autónomo que una mayoría absoluta no sirva de bloqueo para las iniciativas de la oposición

alcancen las cámaras legislativas con mayor facilidad unas reformas que permitan que los ciudadanos participen también en la tarea legislativa y también que controlen cómo vamos legislando los parlamentarios y parlamentarias

y para esta cámara yo creo que tenemos un montón de tareas por delante en el parlamento de españa y también en este parlamento

hoy vamos a aprobar aquí y que haya sido además consensuado por todos los grupos no deja de ser más que un gran paso y positivo eskerrik asko mendia andrea

y es que un estudio elaborado por el consejo general del poder judicial revela que euskadi también es diferente en cuanto al número de causas relacionadas con tipos penales relacionadas con las administraciones públicas en euskadi solo se registran siete causas de este tipo

valencia con doscientos madrid con ciento cincuenta y tres

coincido con el consejero erkoreka cuando dice que siete son muchas causas y que en este ámbito se impone la tolerancia cero

la corrupción preocupa al uno coma uno por ciento de la población

en nafarroa hace cuatro meses a raíz de la toma en consideración de la proposición de ley del grupo socialista

todos los grupos parlamentarios sin excepción manifestamos nuestra preocupación por el distanciamiento que se está produciendo entre la ciudadanía y la clase política a resultas de los casos de corrupción que están aflorando últimamente

el plazo para la presentación de enmiendas en esta proposición de ley

que tendremos ocasión de debatir en la correspondiente ponencia creo que todos los grupos políticos deberíamos compartir también el criterio de tolerancia cero con el infractor desde nuestro punto de vista

necesitamos más actitud y menos pose en el pnv tenemos claro que los primeros que tenemos que actuar somos los partidos políticos apartando inmediatamente de sus responsabilidades al que incurra en actividades ilícitas

puedan acceder a cargos políticos más actitud y menos pose esa es la determinación del gobierno del lehendakari

con la aprobación el pasado veintiocho de mayo del código ético y de conducta

en la vanguardia de la defensa de la ética pública y de la integridad en el sector público todos los altos cargos asesores y directivos de sociedades públicas del gobierno han suscrito el código ético ello implica que su actuación como saben debe inspirarse en valores como la integridad la honestidad o la honradez mientras que su labor

o la transparencia y quiero recordar que este código supera una de las debilidades de los códigos que se han impulsado hasta la fecha y es que los anteriores carecían de medidas de seguimiento y control de las obligaciones además entendemos

la administración tiene que cambiar su actual cultura de organización se trata de ir cambiando la cultura de que el ciudadano se tenga que ajustar a los requerimientos de la administración

la mejor forma de satisfacer las necesidades de la ciudadanía el pnv propugna una administración cercana a la ciudadanía en nuestro

de ley que regule la gobernanza vasca en términos de buen gobierno incorporando entre otros los siguientes aspectos

en la gestión pública la capacidad de participación de los distintos colectivos sociales en el diseño de las políticas públicas y la prestación de información coherente oportuna de alta calidad y rápida los referidos compromisos

a través de la ley de la administración pública vasca que según el programa legislativo aprobado por el consejo de gobierno esta misma semana verá la luz el primer semestre

por lo tanto no va a hacer falta que nadie traiga ninguna iniciativa legislativa en materia de transparencia

por parte de su portavoz el tema de la transparencia vendrá regulada y se establecerán los requisitos en esta ley a la que acabo de hacer referencia

vasca decir recordar que no somos nuevos en cuestiones de transparencia y de participación ciudadana que sabemos cómo hacerlo

eficaz y transparente y una euskadi participativa tenemos sobrada experiencia les voy a volver a poner los ejemplos de bilbao número

número uno también en el de instituciones territoriales

me van a permitir también que les ponga como ejemplo a elorrio que ha sido el primer municipio

administrativa a través del portal de transparencia por todo lo expuesto hemos firmado la enmienda de transacción y animamos al gobierno

buena dirección en la dirección del gobierno abierto besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko

concesiones irregulares apropiación indebida falsedad documental información privilegiada

son el abc de la corrupción política del estado español corrupción que se realiza desde los partidos políticos desde las estructuras internas de los partidos desde las cloacas de esos partidos donde los intereses personales demuestran estar por encima de los intereses de la ciudadanía el servicio de lo público alguno de sus compañeros de partido lo entiende como una carrera profesional

por ello no tienen ningún problema en pasar de lo público a lo privado y además y como se viene demostrando de entrar a los órganos de decisión de las empresas que pagan así los servicios de toda una vida dedicada a defender en lo público los intereses de aquellas empresas privadas ustedes se inventaron los términos de puertas giratorias entre lo público y lo privado

le han dado una vuelta más a ese concepto y lo tienen a nivel penal entran por una puerta y salen al día siguiente por la contraria euskal herria

aquí también priman ciertos intereses y se demuestra que nadie que represente un modelo de gestión público semiprivado

los intereses público privados se entremezclan al igual que las personas que ocupan puestos de responsabilidad primero en el mundo público y más tarde en el privado euskal herria no es ejemplo tampoco de transparencia y de honradez la razón es simple porque aquí tampoco se quiere hoy tristemente conocíamos otro caso más el de la caja de facturas de bidegi en el que se han encontrado facturas por valor de ciento diecisiete mil euros de los cuales

no están justificados con ello se pagaban ropas de bebés

y eso se acaba de encontrar hoy mismo con lo cual todo lo que nos ha dicho anteriormente la representante del pnv

el pnv tiene mucho que aprender todavía en el tema de la transparencia no son ejemplo

y posiblemente habrá que avanzar más y habrá que avanzar entre todos sin ponerse medallitas antes de llegar sobre todo a resolver todos estos problemas que se están encontrando por ejemplo en la diputación foral de gipuzkoa ustedes nos quieren vender hoy un titular el parlamento vasco

y a quién entre otros al gobierno corrupto del estado español que ponga medidas contra la corrupción política y quiénes lo piden entre otros los partidos políticos que ejercen la corrupción en este estado español y es que si llego a saber hoy que venía al teatro hubiese pagado entrada pero

como quisieran ustedes que participásemos porque nosotros no vamos de la mano de aquellos grupos políticos que amparan la corrupción

representan algunas personas de sus partidos

a las empresas constructoras que corrompen y financian sus partidos para luego darles contrataciones en proyectos fraudulentos también para la sociedad vasca como es

obras que están siendo realizadas por aquellas empresas que se dedican a financiar irregularmente por lo menos al partido popular como

algunos representantes de sus partidos representan al sector financiero corrupto especulativo y salvaje a la sociedad y que ahoga a la administración pública ustedes

las bancarizaron hicieron una ley para eliminar o limitar el control público y harán las reformas necesarias para que el poco control público que aún queda sea eliminado y pase a manos de los culpables del mayor expolio al que se ha visto sometida la clase trabajadora vasca la bancarización no es ilegal

ya que va directamente en contra de los intereses públicos personas de sus partidos representan a los partidos políticos que han creado una casta social a la que han llamado clase política que vive por y para gestionar el dinero público y los intereses y corruptelas que se derivan de un sistema democrático

han creado un modelo de supervivencia en el que se protegen entre ustedes y cargan contra el resto ustedes cargan con su policía contra quienes protestan contra la corrupción y protegen a las personas corruptas

regala salidas de la cárcel a los corruptos y encarcela a los que cometen delitos menores derivados de la necesidad ese es su sistema cómo lo quieren cambiar

la corrupción es una consecuencia más de un sistema corrupto es absolutamente estructural y pone a los ladrones y delincuentes a regular los robos y la delincuencia y encima se da a sí mismo la legitimidad de regular las medidas los órganos que vayan a imposibilitar la corrupción política ustedes no se dan cuenta que la democracia representativa en este sistema económico está gravemente herida la política basada en la primacía de los intereses económicos y financieros es el cáncer que la corrompió

sino abrir un nuevo contrato social con la ciudadanía que defina las relaciones políticas y la manera de que esa ciudadanía

para cambiar el modelo político económico y social es necesario una ley de transparencia que ya nos han dicho que no habrá es necesario una ley de código ético que pase de ser una declaración de intenciones

pero más necesario es por lo menos empezar a aplicar las leyes que ya existen castigar los actos de corrupción y encarcelar a los culpables obligándoles

y es que si verdad quieren acabar con la corrupción es necesario cambiar el modelo de gestión público y convertir el trabajo público

económicos que esperan por ejemplo un empleo bien retribuido por ejemplo en un banco besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta en primer lugar agradecer a todos los grupos parlamentarios que han firmado la enmienda de transacción y su voto favorable

decía el señor semper que la corrupción política ha existido existe y existirá y aun siendo esto cierto hay que señalar también que el nivel de corrupción que actualmente hay en españa es absolutamente insoportable y que por lo tanto para acabar con ella lo que hay que hacer son impulsar reformas legales perfeccionar el código penal y hacer que los corruptos

no tanto aprobar determinados códigos éticos que pueden estar muy bien sino sobre todo este tipo de reformas legales perfeccionar el código penal

por lo que han hecho y acaben en la cárcel por lo tanto no me gustaría lanzar ese mensaje ni que nadie lanzará el mensaje de que el ser humano es así

el ser humano también puede impulsar determinadas reformas legales que son las que nosotros hemos hay muchas cosas que se pueden hacer hay muchas cosas que se tenían que haber hecho antes y no se hicieron y todavía quedan muchas cosas pendientes por hacer decía qué es lo que ha pasado preguntaba el señor semper pues efectivamente esto que no se hizo lo que

no hace tampoco demasiado tiempo determinados representantes políticos públicamente venían ha decir que la corrupción política en españa no es para tanto y esto no se puede decir y esto el señor rajoy lo dijo en un debate hace año y medio

que la corrupción política absolutamente insoportable que existe a día de hoy en españa no es para tanto sí es para tanto un caso de corrupción ya es mucho

la situación en la que se encuentra la política española nos pone mucho trabajo que realizar y nos tiene que tratar de impulsar todas estas reformas legales que nosotros planteamos

hace no demasiado tiempo tengo aquí una hoja de un periódico el partido socialista y el partido popular dice el titular cierran filas para que las empresas

no puedan financiar a los partidos políticos depende para qué el partido socialista y el partido popular se siguen poniendo de acuerdo y dice la noticia el gobierno actual impulsó un cambio legal pero de acuerdo con el partido socialista dejó intocables a las fundacione pese al rechazo de partidos minoritarios como izquierda unida

de la semana pasada decía la señora mendia que es un debate más propio del congreso de los diputados yo creo que también es un asunto que tiene que tratarse aquí

al gobierno de españa y al congreso de los diputados a tomar determinadas medidas es una

tan grave como la corrupción política creo que este parlamento también tiene que tener una posición y además porque ha resultado y estoy ciertamente sorprendido un gran avance

han firmado algo que no apoyaron el pasado mes de marzo en el congreso de los diputados estos tres puntos se aprobaron pero

que hoy firman esta transaccional y que van a votar a favor de esas medidas se abstuvieron e incluso si se lee el diario de sesiones alguno de sus portavoces fue especialmente critico

con estás medidas por lo tanto es un gran avance que al menos en este parlamento todos los demócratas estemosde acuerdo en que estas medidas son necesarias y por otro lado

una batería de medidas y reformas especificas que pueden estar muy bien yo le animo a que

creo que ustedes tienen bastantes más parlamentarios que un servidor pueden repartirse el trabajo y todas estas medidas

de discutirlas debatirlas y que se apliquen cuanto antes y decía la señora otadui que euskadi es diferente en euskadi también ha habido y hay corrupción política y desde luego ha habido muchos casos una especie de corrupción soterrada

beneficios y prebendas bajo manga por lo tanto en fin

aquí también ha habido corrupción y todavía hay corrupción y desde luego es indispensable que nosotros también como representantes

lo diga lo diga lo diga y aquí también hay mucho mucho por hacer en todo caso insisto un gran avance una gran enmienda de transacción

esto que aquí se propone no es suficiente hay muchas cosas que se deben realizar por ejemplo una buena ley de transparencia la que se propone aprobar

hace falta una ley de transparencia no la que parece que va a ser aprobada una ley de transparencia que incluya de verdad a la casa real a los partidos políticos

y a todas aquellas entidades que reciben dinero público esto no se hace en el borrador de ley que se ha presentado y que se ha debatido no se hace no se incluye a la casa real no se incluyen a los partidos políticos no se incluyen a los sindicatos a las organizaciones empresariales por lo tanto hay mucho que hacer

una ley de transparencia a nivel nacional y hace falta desde luego una justicia verdaderamente independiente que tampoco la tenemos en españa y hace falta sobre todo y por encima de todo perfeccionar y mejorar la democracia que tenemos a día de hoy en españa y en ese sentido puesto que el objetivo de esta iniciativa

que eh bildu no se sume ya que al fin y al cabo es uno de los mayores símbolos de la peor de las corrupciones pero en todo caso

a los grupos parlamentarios democráticos que han firmado esta transaccional y que finalmente van a apoyarla porque estoy seguro que es un gran paso gracias

gracias señora presidenta en algún momento de mi intervención inicial he hablado de la necesidad de trascender del y tú más yo entiendo que es una tentación a la que algunos

lo único señor maneiro que sí le voy a decir una cosa a mí upyd me merece y usted por supuesto todo el respeto del mundo como cualquier otra formación política democrática pero lecciones lecciones a este grupo parlamentario y a este partido político

cuando usted tenga el coraje que han tenido los miembros del partido popular en la denuncia de la corrupción incluso en la propia podremos hablar de tú a tú porque usted siempre siempre se regodea dando lecciones a los demás pero le recuerdo filesa malesa

afectado por esos casos de corrupción y se cayó no tuvo el coraje para decir ni

cómoda y caliente y ni usted ni su jefa ni su formación política

de los que estamos aquí hoy sentados y lo mismo

yo entiendo que en el manual del buen revolucionario el señor lópez de munain que seguro que lee mucho

hay que leer muchos sabe usted y el manual del buen revolucionario probablemente probablemente usted se lo haya aprendido de memoria pero usted sí que no le afectó ninguna lección de honradez

a usted sí que no se la acepto porque usted habla de estructuras del estado podridas etcétera etcétera

una estructura que fue creada para extorsionar fue creada para secuestrar una estructura que fue creada para amenazar una estructura que blanqueó capitales una estructura que

para financiar una organización terrorista que asesinaba a vascos y usted nunca ha tenido el coraje para denunciarlo

creada para corromper y usted menos que nadie

sobre lo que es el ejercicio honrado de la política porque cuando usted tenga

creadas para corromper a la sociedad vasca y venga aquí ha demostrarnos que tiene esa altura podrá mirarnos a los ojos y hablar de corrupción mientras tanto no tiene ningún derecho desde luego no tiene ninguna legitimidad afronte la corrupción moral

afronte la corrupción moral que eta infligió a esta sociedad afronte con gallardía la que no demuestra hoy ni ha demostrado en el pasado y espero que algún día sea capaz minimamente de demostrar afronte esa cobardía

para corromper a la sociedad vasca y usted insisto ni lecciones de honestidad y mucho menos de ejercicio

lamentablemente el pleno se ha convertido este debate en lo que no queríamos

que era caer en el y tú más o en el adanismo de algún grupo parlamentario que se cree que por tener un nombre nuevo acaban de aterrizar en la política yo creo que además hay una cuestión señor maneiro que también subyace en esta iniciativa no la suya de hoy pero sí en la enmienda transaccional y que es tanto o más importante que la reforma del código penal que es el trabajar en la transparencia solo avanzando en transparencia

podremos atajar a tiempo la corrupción evidentemente se producirán casos

existirá el código penal para sancionarlos de cualquier manera creo que la transparencia

y todo lo que se avance en ese campo debería de ser también por ley para que todos juguemos con las mismas reglas ahora mismo no todos los partidos son iguales y yo creo que eso también subyace o debería de subyacer al menos la voluntad del grupo socialista es esa en esta iniciativa de hoy

que la diputación de bizkaia también lo haya hecho que el ayuntamiento de bilbao también me veo en la obligación de recordarle que el gobierno vasco de patxi lópez pasó como del puesto catorce al puesto uno de transparencia espero que ustedes lo conserven a día de hoy desde luego están suspendidos

refleja la verdadera estructura del gobierno vasco algo tan básico como es euskadinet página punto informativo del gobierno

que hace meses que no actualizan y señores de bildu desde luego ya le ha contestado el representante del grupo popular pero de verdad ustedes lecciones de democracia no pueden dar a nadie y tampoco de corrupción porque la corrupción tiene muchas caras y desde luego ustedes las cumplen todas

o de unos años gracias a todas estas modificaciones legislativas que ustedes hoy no van a apoyar y que su grupo en madrid entiendo que tampoco habrán apoyado habrá

o no lo sean gracias a que se han puesto las prevenciones necesarias para que no lo sean

es peligroso porque te puede caer en el ojo y eso les puede caer a ustedes seguro

asko ayer mismo el senado de brasil convertía el delito de corrupción

sabía qué significaba un crimen atroz y me imagino que ustedes tampoco lo conocerán

las penas de hasta doce años pierden el derecho a la amnistía al indulto y al pago de fianza y tienen mayores problemas para obtener la libertad condicional esto sí parece que son medidas que puedan ir encaminadas a eliminar esa corrupción

ya te las presentaré no te preocupes ustedes lo único que nos

órganos más leyes y más institutos que lo único que están haciendo

que se financian irregularmente los partidos políticos que tienen entre sus bases sociales a personas con delitos de corrupción tengan la legitimidad de controlar esos mismos organismos de control de la propia corrupción ustedes ponen

de que existen dos modelos de corrupción dentro del sistema la corrupción de actos ilegales tipificados en base a la ley y los que son legales pero que no

que aunque pueda ser corrupción pueda ser legal no por ello deja de tener moralmente tiene bastantes consecuencias por ejemplo

por ejemplo otra de las medidas que tiene consecuencias que aquellos altos directivos de los partidos políticos se reconviertan por ejemplo en altos directivos de empresas que pagan así por los intereses por las ayudas prestadas durante años a los intereses empresariales también corrupción porque lo debería ser cómo se ha hecho por ejemplo una ley de suelo que estimula la especulación pública con el suelo y de ahí el precio de la vivienda es financiación irregular es financiación municipal es una financiación de la que se valen los municipios pero no puede ser de ninguna forma

también sería presentarse a las elecciones con un programa y no cumplir absolutamente nada engañando a la ciudadanía es ilegal no pero es un engaño

corrupción es que la gente que eligió un representante político

abandonen ese partido por ejemplo en araba y cito sus palabras porque ese partido es un fraude pues no sé si es corrupción pero un fraude a la ciudadanía alavesa sí que parece ser su partido señor maneiro y luego me gustaría citarles una serie de números setecientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y cinco doce

siete coma cuarenta y siete un millón quinientos ochenta mil setecientos cincuenta y dos coma ochenta y uno

catorce coma noventa y uno esos no son los números de identidad de los políticos

en las cárceles españolas sino que son el dinero que se han levantado en este caso y que se han llevado al bolsillo los máximos dirigentes del partido popular y cuando están hablando de lecciones éticas a mí sí me gustaría también

se ha beneficiado económicamente nunca de su actividad política ninguno de los otros grupos puede decir lo mismo ninguno se ha enriquecido por su actividad política ni ha conseguido

profesional ustedes pueden decir lo mismo no lo creo